la pnl de bildu pide que se deje sin efecto el proyecto de decreto de creación

establecidas en los convenios colectivos euzko abertzaleak tampoco cree que el anteproyecto de decreto iniciado por el anterior gobierno

por lo menos en la forma en que estaba planteado porque no se inició diálogo alguno con los agentes implicados

es qué es lo que pretende bildu que la resolución de los conflictos en relación con los convenios colectivos recaiga sobre el órgano de madrid nosotros no podemos estar de acuerdo con dicho planteamiento hechos como este

por eso presentamos la enmienda a la totalidad instando al gobierno a mantener conversaciones y negociaciones con los representantes sociales para constituir en euskadi

porque entendemos que es imprescindible que la resolución de los conflictos laborales no se solucione desde madrid aprovechemos la posibilidad que deja esta ley recentralizadora

y creemos nuestro propio órgano de resolución de conflictos para ello

dialogar y negociar con los agentes implicados con los representantes de los trabajadores y de la patronal para entre todos conseguir unos mínimos comunes

el momento es grave tal y como han dicho otros representantes con anterioridad y todos hemos de ser conscientes con lo que se avecina si no conseguimos unos acuerdos mínimos creemos

de actuar con plena responsabilidad en defensa de los y las trabajadoras

y lograr unos acuerdos de mínimos que garanticen la continuidad de los convenios colectivos vigentes en euskadi y la resolución de los desacuerdos en un ámbito propio

a los representantes sindicales para que negocien y acuerden porque si bien es cierto que la reforma laboral nos parece muy mala no es menos cierto que existen muchísimos convenios colectivos en euskadi prorrogados algunos incluso

porque no hemos sido capaces de establecer unos acuerdos mínimos para adecuarlos a la situación actual ante esta difícil situación preocupados por el futuro

a conversar y negociar con todos los agentes implicados a fin de evitar que la resolución de los convenios colectivos se haga por el órgano consultivo de madrid

a alcanzar unos mínimos comunes haciendo especial hincapié en que cuando se deje en manos de terceros la resolución del conflicto la elección de dichos terceros sea realizada también

sí gracias presidenta creo que tanto la señora sánchez como la señora

han explicado perfectamente el asunto

de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo es decir la ley de

ha venido criticando de manera contundente lo cierto es que el artículo catorce se dedica a la negociación colectiva a través de ese artículo catorce el artículo ochenta y dos punto tres del estatuto de los trabajadores que se refiere a la posibilidad de inaplicar el convenio colectivo aplicable en una determinada empresa cuando se den las causas fijadas en ese artículo la inaplicación del convenio solo puede afectar a las materias

que en realidad son las más importantes jornada horario sistema de remuneración funciones etcétera para poder llevar a cabo la inaplicación del convenio también llamado es necesario acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores

de consultas a falta de acuerdo en dicho periodo de consultas cualquiera de las partes puede someter la discrepancia a la comisión paritaria del convenio que deberá pronunciarse de siete días si la comisión paritaria no alcanza un acuerdo las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal

por último cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia

colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos en base a este último inciso es donde se sustentaba la propuesta de decreto del gobierno de lópez para constituir una comisión

para que resolviera los desacuerdos relativos a la inaplicación de los convenios cuando

ubicados en euskadi en este sentido conviene recordar que el real decreto ley cinco barra dos mil trece incorpora una disposición adicional sexta que obliga a que las comunidades autónomas se provean del órgano tripartito capacitado para la adopción de la decisión en los conflictos derivados de la falta de acuerdo sobre la inaplicación del convenio

acordando la actuación de la comisión consultiva nacional de convenios colectivos en su ámbito territorial en todo caso de no haberse llevado a efecto tales prevenciones las partes podrán dirigirse a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos

de inaplicación en marzo de dos mil trece se ha firmado el primer acuerdo de colaboración en este sentido entre el ministerio de empleo y seguridad social y la comunidad

por otro lado las comunidades de andalucía cataluña y castilla la mancha han conformado su órgano tripartito propio pensamos que la propuesta

está equivocada o es un error evidente o plantea algo así como la insumisión debería aclararlo creo que la propuesta de eh bildu digamos que no tiene mucho sentido

por el real decreto cinco barra dos mil trece ya que si en el plazo de tres meses no se crea ese órgano será la comisión consultiva nacional de convenios colectivos la que asuma dicha función

creo que no es lo que pretende eh bildu pero es lo que ocurriría

lo que eh bildu propone antes de esa modificación del real decreto cinco barra dos mil trece

en la medida en que si no se creaba ese órgano ni se firmaba el convenio de colaboración con el ministerio se bloqueaba a las empresas radicadas en el país vasco y de manera indirecta se impedía el descuelgue de los convenios si no había acuerdo entre empresa y trabajadores ahora esa posibilidad ha desaparecido por eso digo que tenía sentido la propuesta de eh bildu

era bloquear a las empresas radicadas en el país vasco esa vía e impedir el descuelgue de los convenios si no había acuerdo entre empresa y trabajadores en conclusión y en definitiva y para exponer finalmente la posición de upyd se trata de decidir si se prefiere crear un órgano propio o firmar el convenio de colaboración con el ministerio de empleo y seguridad social teniendo en cuenta que en caso contrario

podrán dirigirse a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos y nuestra conclusión

un convenio de colaboración con el ministerio y no crear nuevos órganos y por lo tanto esa es la posición política de

firmar un convenio de colaboración con el ministerio y no crear nuevos órganos

señora presidenta buenos días a todos señorías una vez más en esta cámara debatiendo de la

introducida por la ley tres barra dos mil doce y en este caso hablando de un punto concreto de la modificación

relativo al régimen de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo

a la posibilidad de esa previsión que

como se ha dicho aquí para solucionar la discrepancia en aquellos procedimientos de solución de conflictos previstos en la negociación colectiva que no sean aplicables o cuando no se haya solucionado finalmente la discrepancia

el supuesto para aquellos centros de trabajo de empresas situados en el territorio de más de una comunidad autónoma y en los demás casos establecía que se recurriría a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas constituidos a tal efecto y

se ha visto que algunas comunidades autónomas o no estaban por la labor

a la constitución de esta comisión y como el gobierno del partido popular no sigue esa estela que siguió en otros gobiernos de no hacer nada

dicho decreto introdujo en la disposición adicional

o puesto en funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la comisión consultiva nacional o suscrito como os he dicho aquí un convenio con el ministerio de empleo

nosotros pensábamos que tras este decreto eh bildu iba a retirar la propuesta porque no parece muy lógico

que prefiera que sea la comisión consultiva nacional la que resuelva las discrepancias y no un órgano

visto que no lo ha hecho pues aquí estamos debatiéndolos y a nosotros a nuestro grupo no nos parece tampoco poco procedente que se constituya comisión en el marco de la comunidad de nuestra comunidad autónoma además porque estaríamos cumpliendo la legislación laboral vigente en este momento y como se ha dicho aquí

o se la recurre como se ha hecho en este momento pero se cumplen se cumple

no va y por lo tanto no vamos a poner objeción y nos parece de acuerdo y por eso estamos

que había propuesto el partido el grupo nacionalista vasco porque nos parecía correcta pero

y no vamos a hacer un ejercicio de ingenuidad política y aquí

denostar la reforma laboral en primer lugar porque yo supongo que eh bildu como todas las normas las considera impuestas

dotando a nuestro marco de relaciones laborales de la flexibilidad necesaria para frenar en un primer momento la sangría del desempleo y con posterioridad recuperar la senda en la creación de empleo porque es más que evidente

es una filosofía laboral con la que este grupo desde luego no está de acuerdo porque ustedes lo que apuestan y muchos de ustedes aquí también lo han dicho es que el modelo laboral

son las culpables de la situación actual y quieren mantener el modelo anterior entre otras cuestiones porque ustedes con esta iniciativa

que no es otra que lab porque evidentemente los sindicatos pierden fuerza con esta reforma y prefieren una legislación laboral rígida

bildu bajo el pretexto y la careta de defender los derechos de los trabajadores y los derechos a la negociación colectiva lo que esconde

que han mantenido durante todos estos años en los procesos de negociación colectiva

posturas maximalistas que ponían en riesgo los propios derechos de los trabajadores y se ha dicho aquí convenios colectivos más de diez años sin poderse llegar a un acuerdo lo que a ustedes no les gusta es la descentralización y la autonomía que posibilita el nuevo marco de negociación colectiva lo que no se ha encajado bien es que ese nuevo texto legal proporciona herramientas para que el tejido empresarial y productivo pueda adaptarse a las nuevas circunstancias económicas con el objetivo puesto en evitar el cierre de empresas

lo que se consagra o lo que se recoge es esa posibilidad en el estatuto de los trabajadores de que se descuelguen del convenio colectivo pero

y esto no es nuevo esto ya estaba recogido por el gobierno socialista en la reforma laboral del dos mil diez porque respondía además a una necesidad

al mercado laboral esa posibilidad recogida en la legislación responde exclusivamente a un planteamiento que no busca sino evitar

la sangría del desempleo y ese modelo de flexibilidad laboral aquí

y tenemos ejemplos de empresas vascas que han acudido a esa modificación de las condiciones de trabajo por ejemplo

redujo el sueldo de sus trabajadores en un diez por ciento por la caída de la actividad o los cooperativistas de eroski donde sus socios con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley acordaron o bien

congelando sus salarios o bien mantener su jornada reduciendo su salario en torno al cinco por ciento

de condiciones del convenio colectivo no es nuevo ya se ha aplicado aquí la flexibilidad

hace mucho tiempo en europa es uno de los pilares de la reforma laboral y es un concepto como les decía importado aplicado e insertado en diferentes modelos laborales europeos como el danés

y cuya traslación y aplicación tardía en nuestro país es uno de los responsables precisamente de nuestra elevada tasa de desempleo

que combina flexibilidad y seguridad aplicado al mercado de trabajo una estrategia política encaminada a lograr un mercado laboral flexible

y que contribuye a que sea más reactivo inclusivo y competitivo y que es un concepto en el que en europa como les decía se viene trabajando hace mucho tiempo alemania

dispone de un marco de relaciones laborales donde la flexibilidad es una de las claves

su baja tasa de paro el modelo laboral alemán cuya principal reforma

posibilita la suspensión temporal de empleo la reducción de la jornada laboral y la vinculación de los salarios a la productividad o podemos hablar de la reciente reforma laboral aprobada por el señor hollande en francia

para mediante los denominados acuerdos para el mantenimiento del empleo se posibilite que el sector empresarial

y a los despidos la diferencia entre esos dos países y el nuestro reside que los agentes sociales a diferencia de lo que ha ocurrido aquí

y colaboraron en la reforma de sus respectivas legislaciones laborales

en términos de empleo lamentablemente para nosotros están a la vista y desde luego desde este grupo parlamentario en lo que no vamos a contribuir como se ha hecho aquí en esa contraposición permanente que se pretende hacer entre el sector empresarial y los trabajadores porque ambos

ambos son imprescindibles para el desarrollo económico social de nuestro país ambos son necesarios si queremos recuperar la senda del crecimiento y por lo tanto

a esa permanente contraposición y confrontación sin empresarios no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa por ello señorías evidentemente no vamos a votar a favor de la propuesta de eh bildu que lo que propone una vez más como decía es esa insumisión legal eso sí en otros nunca en la propia no vamos a pedir que se incumpla la ley

esa comisión nacional lo que pretende es precisamente eso superando

dotar de los instrumentos que garanticen objetividad

que mermen los derechos de los trabajadores nada más muchas gracias eskerrik asko

a la representante del psoe nos ha dado aquí una lectura

agradecemos la explicación pero quiero decirle que ya conocemos bien cuál es el mecanismo y precisamente porque conocemos cuáles son los mecanismos por eso hemos presentado esta iniciativa y con respecto a las reglas del juego es que

no que sean en madrid los que decidan por nosotros y

pues para nosotros por supuesto que es mejor que decidamos aquí pero para tener una comisión en la que se va a aplicar

o las imposiciones que vienen dadas por las reformas del gobierno de madrid

lo que pretendemos es que se proteja la negociación colectiva que al menos hemos mantenido hasta ahora en euskadi y cuando hablamos de negociación colectiva

entre las dos partes afectadas en un conflicto laboral

pues bueno un factor o un componente importante para la mejora de la productividad es el buen clima laboral en las empresas

del buen clima laboral son las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabadores

a la señora llanos me gustaría decirle que me parece una vergüenza el que diga que

la que ustedes han desarrollado y

ha sido consecuente o ha agravado aún más la crisis y la situación que tenemos hoy en día y podría dar mil datos sobre el aumento del desempleo el montón de empresas que se han cerrado los expedientes de regulación de empleo que existen

todo eso ha sido además también por la reforma laboral

por lo tanto pues dejar o querer

cuando para nosotros igual son los bancos el gobierno de madrid y las grandes multinacionales los que han tenido parte

poco con respecto a la enmienda presentada enmienda transaccionada sabemos que se está hablando con los agentes sociales y

es positivo es bueno pero claro el problema aquí es qué pasa si no se llega a un acuerdo qué va a pasar aquí en euskadi

dentro de tres meses se va a llegar a ese

un tercero ya sabemos en beneficio de quienes o quien

lo que nosotros aprobamos fue el inicio os dejamos

si no gusta evidentemente las partes lo pueden cambiar ahí cuando inicias ese proyecto empieza la negociación para ver exactamente cómo puede finalizar o concluir ese proyecto sin más

ha trazado está claro una distinción de trato entre el

y los supuestos de descuelgue salarial o de contenido en aplicación temporal

yo creo que esta reforma introduce en la comunidad autónoma vasca y en toda españa

el convenio colectivo y no es ajeno a ese plan de la reforma laboral

y pretender además reducir el peso la capacidad de organización y de movilización la influencia que pueden tener los sindicatos de clase y quebrar así una línea importante

anula la capacidad de negociación de los sindicatos mediante esta fórmula de descuelgue respecto a lo que se pueden acordar en los

como hemos dicho en cuestiones como salarios horarios y tiempos de trabajo o medidas de conciliación tienen prioridad los convenios de empresa sobre los convenios estatales y autonómicos pero crea con la reforma del dos mil doce este órgano tripartito

al que pueden acudir en caso de desacuerdo las partes pero como a través

modificación que se introduce en la reforma del decreto dos mil trece permite que si no lo hacemos o no negociamos aquí o no se crea ese órgano tripartito aquí las partes podrán acudir perfectamente

a ese arbitraje obligatorio a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos evidentemente aunque en un primer momento

no la paralización porque una paralización en cierta forma implica una insumisión sino la necesidad de poder negociar aquí con todo el tiempo del mundo porque la

a la hora de negociar aquí qué queríamos o no queríamos aquí y teníamos vías suficientes además para poder seguir llegando a soluciones

en estos momentos nos permitía incluso a través de arbitrajes voluntarios

si no se creaba aquí ese órgano el tener que acudir necesariamente a ese arbitraje obligatorio

nos han cambiado completamente a partir de esta modificación del quince de marzo por eso los socialistas vascos consideramos

por lo que la decisión vinculante de un tercero sobre las materias de la negociación supone sí una injerencia sin precedentes

y ataca la autonomía de las partes como nunca antes se había producido pero no puedes evitar evidentemente

y si no nos ponemos aquí a regular o a negociar un órgano en el que se puedan ver aquí en nuestra comunidad autónoma estos arbitrajes

automáticamente y necesariamente tendremos que acudir a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos sin hacer absolutamente nada más pero también creo que nosotros aquí tenemos la posibilidad de poder hacer algo diferente

para las partes afectadas las consecuencias que conlleva lo que ya regula en sí esta reforma en caso

autónoma y además es importante que eso se haga y que sea fruto del consenso de todas las partes

o va a tener muchos problemas de aplicación por eso defiendo la enmienda transaccional que mi grupo parlamentario socialistas vascos ha firmado

dado el alcance que tiene esta medida incluida en la reforma laboral para todos los trabajadores de euskadi

las actuaciones que puedan llevarse a cabo en esta materia señora llanos el que las comunidades autónomas no hubieran desarrollado ya

un órgano equivalente a la comisión consultiva nacional no era una insumisión

de negociación y nosotros estábamos hablando y viendo cómo se podía regular ese órgano no había un insumisión en esta situación pero

para que de aquí al diecisiete de junio lo tengamos hecho

regulemos y lo pongamos en funcionamiento aquí las partes necesariamente tendrán que acudir para

obligatorias a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos no sirve

firmar ahora el convenio con el ministerio de trabajo porque con esperar al diecisiete de junio para qué nos vamos a poner a firmar el convenio ahora mismo lo que tenemos que trabajar es en crear el órgano dentro de nuestra comunidad autónoma y señora zulaika yo no he hablado de productividad así en general

que esta reforma laboral lo que hacía era abandonar la clásica tutela del trabajo por una tutela de la empresa y de la productividad que son dos cosas absolutamente diferentes y concluyo destacando la gran importancia que tiene que mientras tengamos el pronunciamiento

dado que no podríamos evitar tras la reforma que se ha introducido en marzo

pudieran acudir a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos

la que resuelva los desacuerdos en los convenios colectivos que se puedan dar en las empresas en euskadi creemos que es mejor tener un órgano propio el que se encargue de solucionar los desacuerdos cómo

hombre para llegar a acuerdos evidentemente ambas partes tienen que estar de acuerdo y por eso establecemos que por lo menos

unos mínimos comunes en algo en unos mínimos tendremos que avanzar porque es que sino

desacuerdos se van a solucionar allí yo no creo que eso es lo que estaba pretendiendo eh bildu pero desde luego con la forma

en manos de madrid y estoy de acuerdo con la señora

esto tiene que ser un acuerdo entre trabajadores y empresa y creemos que la voluntad de ambos es la que hay que tener en cuenta y también cuando

árbitros si es lo que dice la ley que tiene que ser un tercero el que vaya a solucionar las discrepancias pues intentemos que esos árbitros también sean nombrados

llegar a acuerdos porque la ley está nos guste más o menos o nada como no nos gusta pero es lo que hay

no se consigue nada y tampoco compartimos con ustedes en que la huelga general sea la solución a la resolución de los conflictos que se puedan derivar de los convenios colectivos desde luego ese no es el camino

que qué vamos a hacer de mientras pues ahí está el recurso de inconstitucionalidad y ahí está el intentar entre todos llegar a acuerdos para salvaguardar o para que el daño que esa reforma laboral que no nos gusta sea o haga el menor

a los trabajadores y trabajadoras de euskadi eta besterik ez eskerrik asko

bien no me voy a extender mucho porque desde luego de reforma laboral hemos hablado mucho y seguro que vamos a seguir hablando pero mire

de poner en la boca de los demás lo que no se dice creo que debería de empezar a omitirse

la culpa de la crisis de los cierres de las empresas del paro a los trabajadores en absoluto

tampoco la culpa es de los empresarios evidentemente existe una situación

muy desfavorable una situación económica a la que no se supo enfrentar el gobierno anterior que no solo no hizo nada para intentar aliviarla sino que

agravarla y además y vuelvo a reiterarlo porque yo sí estoy de acuerdo con la reforma laboral dado que aquí todos parece que tenemos que dejar claro en esta sesión y en el diario de sesiones

nosotros sí estamos de acuerdo porque lo hemos dicho aquí antes la destrucción de empleo o sea una de las causas

es el modelo laboral que teníamos un modelo laboral que como yo le he dicho que desde luego no es

del partido popular porque el estatuto de los trabajadores se aprobó en el noventa y cinco siendo ministro

era un mercado absolutamente rígido y aquí desde luego parece que algunos tienen amnesia y lo he dicho en el dos mil diez se empezó con esa senda de flexibilidad

eso lo ha omitido como que la reforma anterior no existía

que existía explicando la reforma laboral del año dos mil diez

se establecía una modificación de los artículos cuarenta y cuarenta y uno del estatuto de los trabajadores para mejorar la flexibilidad interna en lo relativo a la movilidad geográfica modificación sustancial de las condiciones de trabajos suspensión del contrato y reducción de jornada laboral y causas de inaplicación salarial

no fuesen vinculantes para el empresario eso estaba establecido en el año dos mil diez qué es lo que pasaba

no se hacía nada en caso de que no hubiera acuerdo porque eso es muy típico de los socialistas muy típico de un gobierno socialista que es

como la manzana y qué es lo que ha hecho el gobierno del partido popular si no se llega a un acuerdo que esa posibilidad de desacuerdo no sea sine die

y por eso ha establecido la comisión nacional yo lo que no entiendo es por qué ustedes hicieron ese borrador de decreto porque si precisamente lo que querían era que aquí no se aplicase con no haber hecho el borrador habla de poco tiempo que se aprobó en julio del año pasado

ese órgano consultivo en cada comunidad autónoma que algunas ya lo han hecho que no creo que tanta dificultad haya

claro que nosotros estamos por la labor de que eso se haga tras un acuerdo por supuesto las cosas cuando se acuerdan entre las partes son infinitamente mejores pero para acordar hay que tener voluntad de acordar

lo que pasa es que claro y yo lo comprendo porque eso lo de la amnesia del grupo socialista es algo ya coyuntural en su adn las cosas que dicen cuando están en el gobierno

y al revés cuando uno está en la oposición defiende muchas cosas que luego cuando llega al gobierno
son bastantes obviadas mesedez isildu

yo creo que exista este órgano aquí es bueno

pero que es la posibilidad de que no haya un atasco permanente de que

no sea posible y que si no se hace hay una posibilidad de que no haya un atasco permanente

que en europa que en alemania que en francia se acaba de introducir el objetivo que tiene

su puesto de trabajo nada más muchas gracias eskerrik asko

señora presidenta señoras y señores el partido socialista ha presentado una proposición no de ley con el objeto de abordar entre todos esa idea de

la situación presupuestaria del año dos mil trece eleva la importancia de este debate sin recursos no hay política pública

y en lo que representa este parlamento quien administra el setenta por ciento de los recursos y hace las principales políticas públicas en sanidad

investigación empleo infraestructuras no puede estar ausente de la política efectiva de ingresos ni en manos de correlaciones de fuerzas territoriales dispares si lo que se quiere hacer desde este parlamento es una política de país

eso ni lo queremos ni lo proponemos queremos la unidad de acción entre este parlamento y las juntas generales

entre el estatuto de autonomía la ley de territorios históricos y el concierto económico para sumar para hacer país no para rivalizar hacer país es responsabilidad ineludible de este parlamento las leyes y las competencias tienen que servir al interés general de la ciudadanía todo en política debe ser complementario en vez de ser utilizado como arma arrojadiza para que el contenido de la misma

el cien por ciento de los representantes de toda la ciudadanía vasca

de los partidos políticos que están representados en las tres juntas generales luego aquí hay legitimidad política total representación política total

a las competencias de cada cual en el debate y el acuerdo fiscal todas las experiencias anteriores nos llevan a que la armonización fiscal

en los territorios que han desarmonizado unas veces con propuestas fiscales impulsadas por los socialistas otras por el partido nacionalista vasco

tampoco puede ser de recibo que la falta de debate acuerdo y armonización de una política fiscal conjunta para euskadi

de las juntas generales a su falta de iniciativa a su paralización ni a que la armonización pueda estar condicionada

del arco parlamentario los socialistas somos respetuosos con el marco institucional con el nivel competencial de cada institución y precisamente por eso porque nuestra competencia

es por lo que el parlamento se convierte en el lugar necesario y adecuado para debatir y acordar pero el debate principal no es la armonización el principal es qué políticas públicas queremos qué servicios queremos cuánto cuestan quiénes los dan y qué recursos se necesitan

bajo qué figuras impositivas y para qué modelo de sociedad

necesita ser tratado en un lugar que represente al país que tenga visión de país

por el país y esto se hace en el parlamento vasco este debate pone a un lado a quienes quieren seguir en un país

y a quienes queremos avanzar en la igualdad como mejor política de justicia social la falta de una política fiscal para euskadi abortada en este parlamento en dos ocasiones por el partido nacionalista vasco y el partido popular tiene hoy contra las cuerdas a un gobierno que no encuentra apoyo

porque su falta de previsión y de realismo para conseguir y consignar recursos le ha conducido a una infame por antisocial propuesta de recortes

con la mejor de las intenciones en otro tiempo de nuestra historia

que hoy ha sido modificado brutal y radicalmente y en muy poco tiempo a otra realidad que ha venido para quedarse y que necesita de instrumentos de respuesta de instrumentos nuevos como es que la política fiscal

en este parlamento para que cumplamos con la responsabilidad que nos

son las principales preocupaciones de la ciudadanía todas estas preocupaciones conforman las principales políticas públicas a las que tiene que responder

estas materias conforman la actividad principal de las competencias políticas de este parlamento estas materias consumen dos tercios de los recursos públicos del país vasco los recursos nacen de la política fiscal

la política fiscal obedece a los objetivos y decisiones que mediante la política se toman en las instituciones

esta propuesta hoy aquí porque estamos obligados a responder ante buena parte de la ciudadanía vasca sobre cómo vamos a atender sus necesidades presentes y futuras y para alcanzar este objetivo este parlamento debe hacer debates y acuerdos políticos

los tipos impositivos la lucha contra el fraude fiscal la armonización fiscal las exenciones y bonificaciones la presión fiscal que se necesita para los servicios públicos

si la fiscalidad es una de las principales bases para hacer país habrá que asumir que este parlamento tiene que hacer país no se puede ni se debe permanecer ajeno a la fiscalidad

la iniciativa socialista y las enmiendas de totalidad del partido nacionalista vasco y del partido popular sobre los textos se aprecia unanimidad en los siguientes aspectos todos décimos que euskadi precisa

todos décimos que con una presión global equivalente para todos los ciudadanos todos décimos que responda a criterios de progresividad de justicia social de equidad y de eficiencia luego estamos de acuerdo con la función estamos de acuerdo con que la política fiscal

donde no estamos de acuerdo hasta hoy es en qué órgano tiene que dilucidarlo nosotros proponemos que sea este parlamento y de ahí esta iniciativa el partido popular propone que sea en las juntas generales de cada territorio y el partido nacionalista vasco propone

en el órgano de coordinación tributaria lo que propone el partido popular y el partido nacionalista vasco ya se hace ahora lo que hay que medir es cuál es el resultado

da presiones fiscales diferentes da falta de progresividad tributaria da falta de justicia social

esto está dando nuestro sistema fiscal tal como está en estos momentos concebido planteado y funcionando y por este resultado este es el momento de

la propuesta de debatir y acordar la política fiscal en este parlamento el acuerdo del que hablamos en esta cámara de representación de toda la ciudadanía vasca no entra en colisión con las competencias de las diputaciones y de las juntas generales porque el papel de este parlamento acordando políticamente

para su materialización por lo tanto está asegurada respetada la capacidad política de las instituciones forales incluso hay más porque hay quien incluso propone que los acuerdos se hagan directamente

luego quien propone esto ya sabe y ve que la política fiscal para que sea

progresiva necesita hacerse en escenarios amplios más amplios

y siempre con una actitud de colaboración de complementación de sumar que es lo que estamos proponiendo con esta iniciativa los socialistas la propuesta socialista resuelve que haya un órgano donde todo esto se pueda hacer realidad y es este parlamento

de forma participativa la política fiscal tiene además encaje político y jurídico en este parlamento el estatuto de gernika en su artículo cuarenta y uno punto dos dice las instituciones competentes de los territorios

regular dentro de su territorio el régimen tributario atendiendo a la estructura general impositiva del estado a las normas que para la coordinación

y colaboración con el estado se contengan en el propio concierto

para idénticas finalidades dentro de la comunidad autónoma

tres ya establece la coordinación armonización fiscal y colaboración mutua

según las normas que a tal efecto dicte el parlamento vasco

tiene la responsabilidad y la competencia de establecer el marco de coordinación armonización y colaboración en el que las diputaciones y las juntas generales

con ese mismo título y finalidad de ley de armonización coordinación y colaboración fiscal

así lo mandaban otras leyes de mayor rango y el sentido común

sea el órgano común el que vele por la coherencia del sistema fiscal que se aplica en el conjunto de euskadi lo incoherente y alegal es que el parlamento vasco

en un asunto vital para toda la sociedad vasca y que nos encontremos con que casi veinticinco años después de su aprobación la ley de armonización coordinación

al que le han dejado coordinar más bien poco que seguimos sin tener planes de inspección conjuntas por parte de las acciones de las haciendas

y que los ordenadores de sus servicios tributarios como establece el artículo catorce y quince siguen sin estar conectados para luchar con más eficacia

señoras y señores tenemos la oportunidad de poner en marcha una política de país tenemos la necesidad de hacerlo es una necesidad ciudadana

porque son los ingresos los que permiten hacer presupuestos porque no es justo

para la ciudadanía vasca que el proyecto de presupuestos para dos mil trece tenga un recorte de cincuenta y nueve por ciento en el empleo del treinta y ocho por ciento en la vivienda

y del cuatro por ciento en sanidad porque no es justo no es justo que se renuncie en el proyecto de presupuestos de euskadi del proyecto actual

interior el cincuenta y seis por ciento en turismo el cuarenta y nueve por ciento en fondos de innovación el sesenta y tres por ciento en innovación

no son justos los recortes porque se pueden y se deben hacer otras políticas porque hay el marco para hacer

señoras y señores porque es buena para el país hoy esta oportunidad no debe de pasar hoy debemos de aprobar la propuesta de debatir y acordar la política fiscal en este parlamento y debemos mediante ese instrumento y mediante esa acción ese mal rumbo que tiene la política económica y la política pública
establecida en ese proyecto de presupuestos al que le faltan ingresos no porque no los haya sino porque no se han buscado muchas gracias eskerrik asko

una semana más a este parlamento en el que nunca se debate de fiscalidad

semana tras semana usted y su grupo ha tomado usted el relevo

de su grupo en esta materia yo le tengo que decir en este tema y le tengo que reconocer

su nivel de demagogia cada día consigue elevarlo más

y me voy a quedar ahí yo no le voy a explicar por qué es inútil ya sé que es inútil

armonización que no es uniformidad porque sé que lo sabe entonces como sé que lo sabe

no me voy a molestar en explicarle a usted que ha votado usted y su partido toda la fiscalidad de este país de los últimos treinta años que nos venga diciendo como argumento

la armonización entre los tres territorios le voy a decir

le voy a decir por qué por ustedes sabe por qué porque aquí votaron lo contrario de lo que ustedes planteaban en el congreso de los diputados que por cierto también tendríamos que estar armonizados pero les importó un comino y ustedes desarmonizaron gipuzkoa porque les dio la gana

el sistema que tenemos no se puede armonizar hombre si hay un partido relevante como el suyo que incluso gobernando en el congreso de los diputados plantea unas reformas fiscales que como tenemos que armonizarnos las trasladamos los demás aquí aunque no estuviéramos de acuerdo

y van ustedes y votan lo contrario en gipuzkoa

que no funcionan como partido coherente entonces no nos venga a decir la excusa

es el que tiene que decidir porque esto es un desastre de desarmonización

que vota lo contrario en diferentes sitios a lo mismo

no me diga usted que estamos de acuerdo en el fondo pero el problema es que administración si es este parlamento el que decidir o no porque no es verdad

no es verdad que usted persiga una presión equivalente para todos los vascos no es verdad

ustedes han votado lo contrario de lo que viene escrito y de lo que tenemos que cumplir todos en el concierto económico pero es que usted nos viene hoy y voy a terminar porque no voy a perder mucho más tiempo con esto es que usted nos viene hoy a decir y nos dice en su cuarto y último punto

que este tema lo tenemos que aprobar aquí a usted le importa un comino la constitución le importa un comino el estatuto le importa un comino el concierto económico

y entonces ya tenemos aquí las competencias fiscales que no nos dan ni el concierto económico ni el estatuto ni la constitución porque el señor prieto y el partido socialista en euskadi lo ha decidido pues mire usted nosotros

y por lo tanto vamos a votar en contra de su propuesta eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

guztioi egun on legebiltzarkideok eta sailburuok señor prieto el parlamento ha dicho usted que el parlamento no puede estar ausente y no lo está señor prieto la coordinación entre los órganos forales y el parlamento

prevista en el ordenamiento jurídico vigente ya verá como luego siguiendo su propio guión el guión de la pnl que usted ha presentado la proposición no de ley se lo podemos demostrar

otra referencia a una apelación al presupuesto calificándolo como infame propuesta de recortes y no entraré a ahondar mucho en este tema porque no es el objeto de debate ya tendremos oportunidad de debatirlo en una ocasión próxima pero este es un presupuesto el presupuesto que el gobierno ha presentado social el más de los posibles que se ajusta a los recursos económicos de que disponemos como bien sabe usted por último

aportaciones que usted ha hecho en concreto ha dicho que todos décimos

en la función en los objetivos y que

en lo que no estamos de acuerdo es en el órgano competente

se cree lo que usted está diciendo solo estamos en desacuerdo en cuál es

todo lo demás estamos de acuerdo todo lo demás

en esta cámara eso quiere decir que tenemos muchísimas posibilidades de encuentro que tenemos muchísimas posibilidades de llegar a un acuerdo

todas nosotras y todos nosotros es dejar a un lado esos desencuentros que no nos bloqueen y centrarnos en los acuerdos como le he dicho hoy aquí en nombre del grupo nacionalistas vascos defenderé una vez más cuál es posición en relación con los órganos competentes según además el guión que usted plantea en su proposición no de ley euskal

ondoko printzipio eta oinarriak errespetatuko ditu eta berori egokituko zaie las instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener restablecer y regular dentro de su territorio el régimen tributario

y a las que dicte el parlamento vasco para idénticas finalidades dentro de la comunidad autónoma vasca el concierto se aprobará por ley

en cada una de las cámaras de los territorios históricos donde se determina la política fiscal de cada territorio una política

entre los ejecutivos forales y el gobierno vasco a través

creado a tal fin por la ley de armonización coordinación y colaboración fiscal

de acuerdo con las disposiciones citadas la competencia del parlamento vasco

pero partiendo de la premisa el presupuesto lógico jurídico

de que a quien corresponde la regulación de los tributos concertados es a los territorios históricos además la armonización solo tiene sentido cuando la divergencia de regulaciones forales ponga en cuestión que pueda quebrar

de modo que sea necesario establecer algunos principios que corrijan tal divergencia es necesario por tanto demostrar primero que existe una necesidad objetiva de armonizar para luego llevarla a cabo y no solo eso sino que la función armonizadora en ningún caso puede suponer el vaciamiento de la competencia foral legalmente establecida según la sentencia del tribunal constitucional setenta y seis

y la decisión uno barra dos mil once de la comisión arbitral ni la suplantación por el parlamento vasco de las juntas generales de los territorios históricos

corrobora lo expuesto hasta ahora dice en concreto el sistema tributario que establezcan los territorios históricos seguirá los siguientes principios cuarto coordinación armonización fiscal y colaboración mutua entre las instituciones

que a tal efecto dicte el parlamento vasco no admite discusión que si el sistema tributario lo establecen los territorios históricos son ellos

lo cual no obsta a que el parlamento vasco pueda dictar normas destinadas a la coordinación la armonización fiscal y colaboración mutua entre ellos por otra parte el artículo catorce punto tres de la ley de territorios históricos dice

por el parlamento vasco de las normas de armonización fiscal coordinación y colaboración entre los territorios históricos al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarenta y unobia del estatuto de autonomía

regularán de modo uniforme los elementos sustanciales de los distintos impuestos

que he mencionado antes dice en este ámbito lo primero que hay que precisar

la competencia de armonización fiscal que el artículo cuarenta y uno del estatuto de autonomía

exige como presupuesto lógico el reconocimiento de la titularidad de la competencia tributaria en los territorios históricos más adelante esta misma decisión puntualiza que las normas armonizadoras

las demás previsiones sobre la distribución de competencias

cabe concluir que la competencia para mantener establecer y regular los tributos es exclusiva de los territorios históricos por lo tanto

reside en ellos sin perjuicio de lo anterior en tanto que el parlamento vasco también reconocida la potestad de dictar normas para la armonización coordinación y colaboración fiscal puede formular su política para esos fines a través de la ley o leyes correspondientes las cuales en ningún caso puede desvirtuar la competencia foral ni uniformizar la regulación de los tributos aplicando esas conclusiones al caso de la proposición

la falta de fundamento legal del objetivo de atribuir al parlamento vasco que determine una política fiscal para toda la comunidad autónoma cuando resulta que como también dijo la decisión uno barra dos mil once de la comisión arbitral

los tributos concertados si el parlamento vasco no tiene potestad tributaria para crear

cómo se puede declarar o cómo se puede pretender declarar solemnemente

el parlamento será la sede del debate de política fiscal eskerrik asko

observada la propuesta original del grupo socialista y las enmiendas planteadas por el grupo nacionalistas vascos y el grupo populares vascos llegamos a la conclusión

en uno de los puntos todos ellos dicen lo siguiente el parlamento vasco considera que euskadi precisa un sistema tributario armonizado

para todos los ciudadanos de euskadi y que responda a criterios de progresividad justicia y equidad tanto en la recaudación en la distribución de los recursos es decir los tres partidos políticos están básicamente de acuerdo en qué es aquello que euskadi y los ciudadanos vascos necesitamos

armonizado el partido popular acertadamente añadía en su enmienda que esta presión equivalente no solo debe ser para todos los ciudadanos de euskadi sino también

es decir mejoraba de este modo el texto original y la propuesta original recogida en el punto uno de la iniciativa original del grupo

esta leve mejora que introducía el grupo popular desaparece de la enmienda transaccional no se lleva a la enmienda transaccional firmada entre el grupo popular y el grupo nacionalistas vascos en todo caso lo que parece obvio

ni el grupo populares vascos ni el grupo nacionalistas vascos cuestionan tanto como deberían el actual modelo institucional y fiscal vasco tampoco

y el grupo socialistas vascos añade que debe ser en el parlamento vasco en base a la legalidad vigente donde debe debatirse y acordarse la política fiscal

es recordar la legalidad vigente para decir que ya podemos debatir y acordar la política fiscal en el parlamento vasco

citan la constitución española el estatuto de autonomía y la ley del concierto económico para explicarnos que debe ser en las juntas generales de los territorios históricos

la política fiscal para los ciudadanos vascos y consideran que este entramado permite perfectamente los objetivos arriba señalados

una presión fiscal global equivalente para todos los ciudadanos nosotros como siempre hemos venido defendiendo pensamos que el objetivo debe ser efectivamente

para el conjunto de los ciudadanos vascos pero también una sola política fiscal para el conjunto de los españoles y una sola política fiscal al menos en la base para el conjunto

que los ciudadanos vascos paguemos distintos impuestos en función del territorio histórico en donde residamos y este principio lo defendemos siempre

a diferencia de otros grupos políticos este principio que nosotros consideramos fundamental lo defendemos en esta cámara y lo defendemos también en el congreso de los diputados es un absurdo que los ciudadanos vascos paguemos distintos tributos distintos impuestos

distintos tributos en función de la parte de españa donde residamos y precisamente por esto proponemos modificar

el actual sistema en más de una ocasión hemos propuesto como ustedes perfectamente saben impulsar todas las modificaciones legales que sean necesarias para lograr

y garantizar de ese modo la mayor igualdad posible para el conjunto de los ciudadanos por lo tanto nosotros a diferencia del resto de grupos sí cuestionamos el actual sistema y sí queremos cambiarlo la iniciativa del grupo socialistas vascos nos parece insuficiente por cierto algo curioso el partido popular y el partido nacionalista vasco defienden este modelo

y con una presión equivalente para todos los ciudadanos cuando está perfectamente demostrado que el sistema que tenemos

justo lo contrario de lo que ustedes consideran que es necesario es decir es este modelo disparatado el que facilita la desarmonización

el que permite que el partido socialista de euskadi desarmonice aquí o allá o lo hagan el resto de partidos políticos pero es este sistema el que permite

ha recordado que en los últimos tiempos ha habido desarmonización en euskadi pero ha habido desarmonización porque el sistema lo permite lo facilita

que es imposible debatir seriamente sobre la fiscalidad en euskadi sin al menos mencionar y en nuestro caso criticar el disparatado modelo institucional y fiscal

que una comunidad autónoma como euskadi de apenas dos millónes de habitantes tenga cuatro parlamentos

al margen del control del parlamento vasco y que carece de sentido que existan en euskadi tres políticas fiscales diferentes

pague distintos tributos en función del territorio histórico donde resida por las mismas razones que es absurdo que un ciudadano español siguiendo los mismos principios

diferentes impuestos en función de la parte de españa donde y defendimos también en ese pleno que las competencias fiscales residan en este parlamento

no lo ocultamos consideramos que debamos avanzar hacia una sola política fiscal

amplios a los que se refería el señor prieto

no solo rompe la igualdad sino que el echo de que existan tres políticas fiscales diferentes

alcanzar la mejor política fiscal posible porque es habitual que ocurra y así ha ocurrido históricamente que cada territorio histórico utilice su política fiscal

y criticamos siempre lo hemos hecho en solitario desde el primer día de presencia institucional de upyd en este parlamento el sistema de concierto económico y el cálculo del cupo porque este sistema y este cálculo nos privilegia a los ciudadanos vascos al sobrefinanciarnos de los restantes ciudadanos españoles y nosotros estamos en contra de todo tipo de privilegios incluso cuando esos privilegios pudieran favorecernos entiendo que los partidos conservadores aquí presentes defiendan privilegios para sí mismos pero es ciertamente poco entendible que partidos políticos que se llaman progresistas sigan defendiendo

y el cálculo del cupo porque insisto es un sistema que nos sobrefinancia respecto a los ciudadanos españoles y nosotros no queremos ningún tipo de privilegios

y lo denunciamos en cualquier parte de españa por tanto nuestro sistema es modificar un sistema opaco confuso poco transparente ineficaz e ineficiente que provoca disfunciones y duplicidades y que evita

fiscal posible y que provoca desarmonización es este sistema el que provoca desarmonización

en un territorio u en otro provoquen desarmonización por lo tanto es este sistema modificarse la iniciativa del grupo socialistas vascos es insuficiente pero supone un paso supone un paso

para cuestionar supone un paso también para cuestionar

e impulsar el debate de su necesario cambio y un paso también para cuestionar la existencia del concierto económico y todo este

que sufrimos es por esto por estas razones políticas que votaremos a favor de la iniciativa original nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

se abrió la puerta a una serie de consideraciones políticas que debemos atender

es la que propone la proposición no de ley presentada por el grupo socialistas vascos en gran medida sorprende al leer las enmiendas y la enmienda transaccionada al resto de los grupos que diciendo lo mismo unos y otros entendemos cosas absolutamente diferentes sobre fiscalidad y ya ni hablamos cuando nos referimos a progresividad

esta es la consecuencia directa de vaciar de contenido las palabras en política así incluso cuando se habla del mantenimiento de los servicios irrenunciables por parte del sector público

aunque podemos identificarnos con algunade las iniciativas presentadas los actores de la misma por lo menos nos obligan a tomar ciertas reservas errealitateak

boluntaristak badirela baina ez direla eraginkorrak izaten no voy a entrar a valorar los presupuestos ya que no toca pero sí diré que los ingresos y las políticas de ingresos fiscales

el modelo fiscal que se implementa y sobre quienes recae el peso de la fiscalidad es incluso una de las maneras de distinguir más allá de nombres y siglas la ideología de unos u otros

ya sé que dirán ustedes que este discurso está ya superado y no es el momento de las ideologías sino de las soluciones pues así es cada una de las ideologías aporta soluciones y estas además son muy diferentes y para ejemplo gipuzkoa y así

en los criterios que fijan y delimitan claramente los artículos cuarenta y uno punto dos del estatuto de autonomía

y el artículo catorce punto tres de la ley de territorios históricos y aplicando lo que dice la ley vasca de armonización y ha de ser solo y únicamente en esos términos ya que en los términos exactos los límites que imponen estas normativas son clarísimos y no dejan espacio a ningún tipo de interpretación que no sea la queda reflejada sobre el papel en definitiva

y del respeto al actual marco de competencias de las mismas en materia fiscal ya que en ningún momento las ponemos en duda

en el que recae el monto más importante del gasto público total del dinero recaudado por las diputaciones forales

del sistema tributario de los territorios históricos ejercer la coordinación armonización fiscal y colaboración entre las instituciones de los territorios históricos según las normas que a tal efecto dicta el parlamento esto no lo digo yo lo dice la ley del concierto económico

también se está tratando de la armonización fiscal tema que incluso en la ley de armonización coordinación y colaboración fiscal aprobada por este parlamento se define como un punto problemático y por ello lo define de una manera clara en su desarrollo y dice lo siguiente con la armonización no se trata de alcanzar la misma vía de la uniformización de toda normativa que deba emanar de los órganos competentes de los territorios históricos

no se trata de evitar toda posibilidad de diferenciación de un sistema tributario con otro sino de establecer las líneas básicas por las que se deben desenvolver los mismos ildo horretatik

sobre fiscalidad y dar su opinión y marcar las líneas básicas pretendemos traer a esta cámara una herramienta básica necesaria que posibilitara fijar también posiciones claves en los ingresos para definir el conjunto del gasto final que se abordará en el debate presupuestario anual

mantenemos y defendemos todas las reformas que esta institución ha implementado con resultados favorables que no solo son evidentes sino también demostrables y es que en definitiva el modelo fiscal y la política fiscal que se ha puesto en marcha desde gipuzkoa funciona y verdaderamente aporta contenido a las palabras de progresividad equidad y justicia

lo que tiene que ver con la fiscalidad que llega a esta cámara ya que lo único que hace falta es voluntad política para hacerlo ya que las herramientas las tenemos

sino sobre la voluntad política de utilizar lo que existe o no hacerlo

y de utilizar todo lo que está en nuestras manos para acabar con las políticas de recortes y avanzar en la política de los ingresos eskerrik asko eskerrik asko

presidenta cualquiera que quisiera hacer

se dará cuenta que este no es un debate ajeno a la realidad

inmensa mayoría de los partidos políticos con responsabilidades de gobierno o con responsabilidades institucionales en el país vasco si cogiéramos esa hemeroteca veríamos que ha habido propuestas de muchos tipos para hacer debates de políticas fiscales y acuerdos sobre la política fiscal entre otras cosas porque la experiencia del país vasco es una experiencia que ha tenido sus problemas

desde que nacieron aquellas famosas vacaciones fiscales hasta ese impuesto de sociedades que llegó a ser diferente en los territorios del país vasco

y de otros por lo tanto todo eso ha ido marcando por un lado una necesidad de hacer una política fiscal de país pero sobre todo

esta nueva situación económica esta situación de crisis económica lo que se ha abierto es mucho más

en el que es imprescindible que haya si se quiere hacer país y si se quiere mirar hacia el conjunto de la ciudadanía que haya una política de obtención de recursos adecuados para que ese país se pueda estructurar se pueda hacer

de acuerdo con los criterios mayoritarios que se puedan acordar en ese país esta es una realidad tan

presupuestos en el proyecto de presupuestos para el año en curso que como antes he citado innumerables son los recortes innumerables son las

para la economía tan necesaria para salir de la crisis económica

aquella institución que tiene la obligación de velar por el conjunto de la ciudadanía en las materias esenciales de atención pública a esa ciudadanía que es el gobierno vasco y que es este parlamento vasco y que

y que como digo da las principales atenciones

a la ciudadanía sea quien tenga que hablar de la política de ingresos porque no es posible en diferido hacer una política para todo el país no es posible

buscando el protagonismo político en los recursos públicos en la política fiscal en la política de ingresos yo creo que esto es tan evidente que hay incluso quien ha propuesto

en una mesa camilla y que hablaran hasta llegar a una propuesta de acuerdo en política fiscal bueno ha habido de todo tipo de

ningún órgano o ningún organillo tenemos la institución es el parlamento

a lo que convocamos los socialistas es a que en función de la capacidad jurídica pero sobre todo en función de la capacidad política podamos hacer ese debate y ese acuerdo de política fiscal y quiero remarcar esto porque lo quiero hacer con mayúsculas es que queremos debatir y acordar

y ese espacio luego se desarrolla se desarrolla legislativamente donde tenga que desarrollarse unas veces se podrá desarrollar aquí en función

en las instituciones forales se tendrá que desarrollar donde corresponda pero políticamente

la oportunidad y la necesidad tenemos la obligación es que tenemos la obligación de hacer país de gobernar para todo el país de producir políticas públicas

de buscar de encontrar y de consignar aquellos recursos que necesitamos yo comparto cuando el señor maneiro dice que la fiscalidad necesita espacios

intervención claro que sí como mínimo aquellos espacios económicos y sociales donde hacemos nuestra vida tendríamos que ir a espacios mucho más amplios lo que ocurre es que este parlamento tiene

y como efectivamente queremos incluso hacer las dos cosas

para poder hacer debates poder decidir aquí qué política queremos hacer y después llevarla

hasta los ciudadanos en la manera que corresponda y por eso yo

tanto la posición de upyd como la posición de bildu vayan a permitir dar este paso dar este avance que lo hacemos como se ha podido ver aquí

que tienen sus distancias y que tienen otros objetivos pero que nos permiten sumar porque esto es la vocación fundamental de este parlamento poder sumar entre diferentes para convivir para hacer políticas para el conjunto de la sociedad

compartir entre diferentes espacios que nos puedan hacer recorridos comunes para beneficio del conjunto de la ciudadanía y esto es lo que realmente se está

a los dos grupos creo que tenemos

tenemos bastante en común como he podido apreciar por las cosas que ha dicho incluso por la propia enmienda que se plantea

un paso adelante y esta es la diferencia pero no tengan ningún miedo ninguna preocupación porque se van a encontrar muy a gusto en este paso adelante y sobre todo se va a encontrar muy a gusto quien tiene la obligación de hacer política para todo el país que es este gobierno que

proponer a los ciudadanos vascos una serie de políticas que hoy son claramente insuficientes

se necesita una política fiscal y unos recursos diferentes por tanto yo creo que estamos en una buena posición y señor damborenea
lamento prieto jauna amaitzen joan lamento no poder decirle nada porque nada ha dicho usted luego no puede haber respuesta

que respetamos y estamos de acuerdo con el estatuto de autonomía que respetamos y estamos de acuerdo con el concierto económico

en todo algo sí que le he dicho no deja de ser curioso

que van a votar a favor de que este parlamento tenga competencias fiscales que ninguno lo plantea

que es en el congreso de los diputados sean tres partidos en donde hasta yo recuerdo upyd ha planteado siempre la derogación

competencias aquí en las juntas generales o en cualquier sitio que sea el partido socialista que recuerdo su votación

el que votó en contra el que votó en contra

el que nos venga hoy a decir que es que este parlamento tiene que decidir y votar las competencias fiscales

que tres partidos que no se han caracterizado precisamente por estar a favor del concierto económico

el que tiene que aprobar las normativas fiscales y digo curioso porque el señor maneiro por lo menos ha sido claro dice esto es un avance para suprimirlo pues es posible es posible y yo ahí es probable que le dé la razón a usted es un

la supresión del concierto económico y con su apoyo y algunos más pues incluso hasta lo mejor convencen a algunos de los de mi grupo para que lo hagan la uniformidad y la igualdad que es muy progresista y muy de izquierdas

dentro de mi partido yo

tres modelos fiscales distintos es mentir es mentir no tenemos tres modelos fiscales distintos o que venga el señor de bildu diciendo que está encantado con la propuesta fiscal de bildu en gipuzkoa porque es superprogresista pero si le falta a ustedes por subir a las rentas altas en el irpf por lo menos cinco puntos para igualarle a mariano rajoy

cinco puntos más en el irpf para las rentas más altas que la que ustedes tienen en gipuzkoa

por cierto de qué estamos hablando

de qué estamos hablando aquí la única desarmonización de verdad que ha habido es cuando algunos decidieron que en gipuzkoa

el de patrimonio que el partido socialista había decidido que en el resto de españa ya no se cobraba

y eso no solo era desarmonización fiscal

de muchas diferentes formas nos dice el señor prieto

las vacaciones fiscales las votó el partido socialista creo que es una de las pocas votaciones

votaron ustedes a favor en los tres territorios y me acuerdo perfectamente porque nosotros no votamos a favor porque nos parecía que era una desigualdad frente a las empresas que ya estaban trabajando pero ustedes son los que votaron a favor

plantean esto porque están buscando el acuerdo en política fiscal no es se lo dije hace dos años cuando ustedes estaban en el gobierno nosotros les propusimos llegar a un acuerdo en materia fiscal seguimos esperando las propuestas del partido socialista ni una sola vez han presentado una propuesta de reforma de ningún impuesto ni en esta cámara

nos vienen diciendo que es muy importante pactar la política fiscal se niegan ustedes a pactar nada ustedes han hecho un banderín de esto

y algunas veces también el viernes tenemos que debatir de este tema ahora yo no sé si después de esta votación y según el señor

y después de esta declaración que van a hacer ustedes y los más favorables del concierto económico de que es este parlamento el que tiene las competencias fiscales

tenemos un modelo fiscal vasco donde los órganos competentes para regular la política fiscal son

un único un sistema un modelo fiscal vasco señor maneiro el modelo

es el que permite la desarmonización dice usted este

que usted califica como tal es un modelo vigente durante treinta años un modelo que se ha mostrado válido un modelo que se ha mostrado muy

y que tal vez en algunos momentos efectivamente haya que modificar algunos aspectos pero el modelo es válido y eficiente durante treinta años ha sido un modelo válido y eficiente el señor prieto ha querido o ha mencionado alguna de las excepciones

cuando un modelo que lleva vigente tantos años cuando ante un modelo uno puede decir y contar

dedos de una mano cuantos problemas ha habido

quiere decir que la ley que la generalidad es muy buena cuando la excepción es lo que se narra quiere decir qué es eso una excepción y por tanto

además por cierto otra de las fortalezas del modelo es que esas posibles desarmonizaciones

todavía es más perfecto el modelo usted señor prieto decía

adelante que demos un paso más adelante que nos sentiremos más a gusto pero bien sabe usted

cogerles el paso pero bueno nosotros seguiremos intentando lópez de munain jauna zuk

esan zenuenean tras el debate sobre fiscalidad celebrado el pasado quince de marzo

zuk orduan esandakoarekin y no es casualidad que durante la semana pasada algunos de los portavoces de los partidos políticos aquí presentados

de una cierta dejadez a la hora de aflorar el fraude la intención de estos grupos a qué grupo se refería usted señor no queda clara ya que por lo que parece no se sabe muy bien

o por lo contrario intentar modificar por la puerta de atrás el sistema vasco de fiscalidad modificando a los actores de dicha recaudación fiscal

presidenta nos ha costado

pero creo que lo estamos consiguiendo estamos consiguiendo con un solo parlamentario que efectivamente esta cámara y la sociedad perciba cada día que pasa con mayor claridad que el modelo que tenemos

el modelo institucional que tenemos y el modelo fiscal que tenemos es absolutamente disparatado

nuevos pasos para abrir o impulsar este debate

satisfechos en lo que a upyd corresponde yo decía que esta iniciativa es claramente insuficiente porque aquí hemos hablado

ha mantenido unas posiciones muy claras hay que modificar la constitución española

hay que modificar la ley de concierto económico y hay que suprimir el concierto económico para alcanzar un modelo mucho más razonable y mucho más acorde con el siglo veintiuno yo no sé si exactamente decía que tenemos tres modelos fiscales distintos esto decía que decíamos el señor damborenea desde luego

que no es ni valido ni es eficiente y que nosotros queremos cambiar siempre lo hemos dicho siempre lo hemos defendido durante estos cuatro años

a día de hoy tres políticas fiscales distintas

que queremos cambiar porque provoca desarmonización y desigualdad

a favor de la igualdad de los ciudadanos dentro de euskadi

y en el conjunto de europa con estos principios que siempre hemos defendido

la modificación de la constitución española del estatuto de gernika y de la ley de concierto económico

la supresión del concierto económico y el cálculo del cupo porque provoca sobrefinanciación sobrefinanciación a quién a los ciudadanos vascos privilegios y nosotros estamos en contra de cualquier tipo de privilegio

que supuestamente nos puedan beneficiar pero que

se van a acabar porque lo mejor para todos no es que haya una parte de la sociedad que tenga privilegios lo mejor para todos en el medio

igualdad posible por lo tanto nuestra coherencia está fuera de toda duda cada grupo político que vaya a votar a favor de esta iniciativa

habrá explicado o explicará por qué la vota tendrá sus razones

determinadas incoherencias de determinados grupos puedan verse muy claramente en este pleno no es así en el caso de upyd creo que la coherencia es

esta iniciativa lo cierto es que nosotros esta misma iniciativa ya la votamos a favor en el pleno monográfico en aquella votación que resulto

se había llegado a una enmienda de transacción enmienda de transacción que luego se retiró como consecuencia de lo cual esta iniciativa decayó pero ya apretamos el botón del sí porque consideramos que es un paso por eso votamos esta iniciativa porque es un paso un pequeño

sirve además para cuestionar el modelo institucional que tenemos el modelo fiscal que tenemos incluso la propia existencia del concierto económico el cual no tiene ningún sentido en el siglo veintiuno no va a tener ningún sentido en el corto plazo en la españa actual y no va a tener ningún sentido y ningún futuro

en esa europa con una sola política fiscal en esa europa de ciudadanos sin fronteras interiores y con la máxima igualdad posible el concierto económico se va a acabar ciertamente y nos alegramos de que este tipo de debates

sirvan para dar pequeños pasos en esa dirección en todo caso nosotros además de votar

legales radicales en el sentido de que van a la raíz de los problemas

para defender siempre y en todo lugar con los mismos principios y con toda la coherencia la máxima igualdad posible para el conjunto de los ciudadanos

las razones por que debamos dar como grupo euskal herria bildu explicaciones o no de una votación que en este caso es lo hemos decidido estaba ya en el anterior en el pleno monográfico como ya se ha explicado anteriormente

todos sabemos por qué en ese caso y en aquella ocasión no salió aquella

a un acuerdo o entendamos de una manera u otra lo que pone en un texto

armonización y uniformización es decir no es lo mismo lo hemos explicado lo hemos explicado y lo explica incluso la propia ley y lo he leído

las políticas fiscales de mariano rajoy o en este caso también podríamos hablar de las de diputación foral de bizkaia

en el caso del partido popular tampoco se habla de la amnistía fiscal

y es que claro poner ejemplos es muy fácil pero es que todos también tenemos nuestra historia detrás y todos sabemos

si usted trae para debatirme unas palabras mías en un pleno que era totalmente diferente

y de lo que las diputaciones o las juntas generales hacían en relación a ese fraude fiscal

lo que hemos presentado anteriormente simplemente para darle a ustedes una colleja pues

por la política fiscal que han llevado durante todos estos años sí se lo décimos claramente

y es que además ustedes y esto sí en un debate que sí viene a relación ustedes ahora nos hablan de

la fiscalidad debe servir para redistribuir eficazmente la riqueza entre la población en un ejercicio de progresividad y de justicia social y está muy bien y suena muy bien de verdad pero es que claro según para

todo este parlamento seríamos una pandilla de progres y de populistas y eso lo dicen ustedes también eso está también

a los que más tienen es populismo y es

de qué están hablando cuando hablan de las tres cosas que son en las que todo el mundo

nosotros solo venimos a decir aquí y es lo que hemos dicho

no solo hablar de los gastos de los presupuestos sino también hablar de las posibilidades sobre los ingresos

un día y otro es de los recortes eskerrik asko

de esta enmienda transaccional gracias de la enmienda arazorik egin daiteke